en definitiva con nuestra propuesta queremos por un lado rechazar unas palabras que independientemente del contexto en que se dicen muestran poca

en una materia especialmente sensible como son las condiciones laborales y las condiciones de vida de la juventud de nuestro país palabras por cierto que contradicen a otras que el consejero toña hizo el año pasado invitando a las y a los jóvenes a resistir y aguantar y no salir al extranjero palabras que son el reflejo

han estado desaparecidas tanto a nivel discursivo como presupuestario urge dar la vuelta a la situación y empezar de verdad a construir unas auténticas políticas integrales de juventud los datos la demografía el presente y el futuro así lo demandan zuzenketei erreparatuz eajren

me parece que voy a ser políticamente incorrecto en esta intervención porque además yo no soy joven ni voy de joven pese a que sé que vivo en una sociedad que hay unos que son jóvenes perpetuos pese a que cumplan una riada de años

muy importante nosotros como partido como grupo lo hemos planteado hace al principio de esta legislatura de la anterior de la anterior

bastante solos no es la primera vez que los jóvenes vascos

yo como no soy joven pues tengo memoria y yo conozco lo que pasaba con los de mi generación en mi cuadrilla hubo dos que estudiaron ingenieros

y viven en estados unidos hace unos veinticinco años otro estudió arquitecto y vive fuera otro estudio medicina y se fue a madrid

no porque no querían volver porque no había condiciones para volver porque cuando alguien sale y trabaja pues al final chico conoce chica la gente hace su vida sí claro la gente hace su vida la gente quiere seguir hacía delante la gente quiere formar su familia

y cuando dicen queremos volver pues nunca se da esa oportunidad

pero que hoy es imposible porque hoy trabajan los dos porque si no trabajan los dos lo tienen más difícil la diferencia es que antes se iban a madrid o a barcelona

de la generación de mis hijos conozco a gente en berlín

en madrid en dublín en yakarta en emiratos en estados unidos

y que evidentemente va a ser todavía más complicado que puedan volver y por eso digo que el tema en fin es bastante serio yo no conozco a ninguno de todos los que salieron

que haya podido volver porque nunca encontraban nada en condiciones similares para poder volver

en este país llevamos exportando gente en estos últimos treinta años

en estos años seguimos siendo los mismos que hace treinta años más viejos todos verdad y el problema no son las declaraciones más o menos afortunadas del lehendakari o del consejero que también hizo algunas el año pasado sobre esta materia

que las declaraciones del lehendakari es bueno que los jóvenes salgan fuera y se formen y tengan más

por supuestísimo incluso hay gente que paga los que pueden pagan para que sus hijos

el problema de nuestros jóvenes hoy no es ese

salen fuera porque van a mejorar su experiencia y luego van a venir aquí para tener contratos mejores no salen fuera

porque aquí esos jóvenes cualificados no tienen posibilidad de trabajar y lo peor de todo de los que yo conozco

es que ni siquiera se plantean porque los de mi generación se planteaban todos que querían volver

dan por supuesto que no van a poder volver y el tema no es

el tema es aquí hacemos políticas económicas de verdad desde hace tiempo para crear puestos de trabajo ojo de los buenos

vienen empresas se crean nuevos puestos de trabajo o estamos esperando a que nos jubilemos los de los sesenta y entonces se van a producir un mogollón de vacantes

y entonces ya el paro juvenil va a acabar porque claro

pues va a haber nuevos puestos de trabajo que ni siquiera van a ser los que existen hoy señor lehendakari ni siquiera van a ser los que existen hoy

planteó un programa que se llamaba para repatriar jóvenes talentos

cuál es el éxito y qué es un joven talento un joven talento es un joven que se ha ido a trabajar fuera porque fuera le ofrecen

pues no sé si es joven talento o no es joven talento lo del talento cada uno lo mire como quiera yo

que se lo dijimos al principio de esta legislatura que el principal problema que tenemos como viabilidad de país

oiga y el que no es nacionalista soy yo porque todos esos jóvenes que están trabajando fuera

en esos países y a la seguridad social de esos países y pagan impuestos en esos países ahí aquí no aquí no está ocurriendo eso y cuando se nos plantea que esto se soluciona con una ley de la juventud pues uno alucina ya en colores porque si ahora el empleo lo vamos a crear con leyes

pues vamos a crear mañana por urgencia artículo único está ahora de moda vamos a crear dos millónes de puestos para jóvenes

por unanimidad y ya hemos resuelto el problema y este no es un tema de juventud

ya no estás hablando de un joven estás hablando de una persona mayor con un proyecto de vida que quiere vivir su vida independiente y eso hay que poder facilitárselo aquí y la gente se va fuera porque aquí no está lo malo no es que no esté

es que no se espera y por eso nosotros le planteábamos a este gobierno hace cuatro años y hace tres y hace dos que había que instaurar políticas para darle una vuelta a la estrategia económica que llevamos

hace unos cuantos años el propio partido nacionalista vasco se encargaba de hacer políticas

últimamente se encarga de hacer políticas que parece que no solo no atraen empresas sino que hay empresas que se deslocalizan fuera

si aquí vamos a seguir subiendo los impuestos y vamos a subir el ibi y vamos a subirlo todo porque claro como al final cotiza cada vez menos gente ustedes van a conseguir algo que tiene su curiosidad

a este paso en uno de los asilos fantásticos de europa con un pequeño problema no sabemos quién va a pagar a los cuidadores

con los impuestos que hay que recaudar con puestos de trabajo bien remunerados y señor lehendakari

pero si hubiera que reprobar a este gobierno por algo es por incumplir sus propios presupuestos la no ejecución de las partidas destinadas precisamente a los emprendedores en esas declaraciones también hablaba el lehendakari de los emprendedores tenemos la ley de emprendizaje

todas las propuestas económicas contempladas en sus presupuestos la ejecución ha sido cero sí sí sí

inejecución las inversiones reales inejecución lo que en el presupuesto crea empleo inejecución

el doble de paro que al principio de la legislatura lo cual da la sensación

de que la economía va al margen de lo que plantea el gobierno eskerrik asko damborenea jauna

sí gracias presidenta y buenas tardes a todos efectivamente lo que el grupo socialista tiene claro es que este gobierno no desarrolla políticas de juventud
hace grandes titulares habla de programas habla de planes nos habla

emprendedores de estas cosas que nos habla el señor damborenea pero que a la hora de la verdad

a la dirección de juventud del pnv que es la transversalidad la política de juventud es una política transversal que podemos encontrar en todos los departamentos pero que realmente no termina de concretarse en nada y realmente no lo dice el grupo socialista porque aquí es verdad que todavía no lo ha dicho nadie pero en este parlamento llevamos trabajando unos meses en una ponencia de juventud que

pero en el que han acudido muchos colectivos para hablar cada uno en el ámbito en el que se desarrolla siempre relacionado con la juventud

que intenten resolver el problema de la juventud y hoy nos encontramos aquí ante una moción que presenta eh bildu intentando no sé si resolver nada porque lo de los cumplimientos con ustedes no va pero al menos poner

un poco que es lo que está pasando efectivamente en esa ponencia no hay nadie

que haya dicho para bienes de lo que está pasando con este gobierno

la juventud es ese colectivo que claro le afecta el empleo

y por tanto es la escusa perfecta para hablar de esa transversalidad pero no terminamos de concretar en nada el diagnóstico todos los compartimos todos estamos rodeados de gente joven aunque yo señor damborenea me definiría como una persona joven

y sabemos los problemas que hay del acceso laboral que a partir de ahí salen todos los demás

y todo lo que esto conlleva y entonces usted señor lehendakari en unas yo creo que afirmaciones desafortunadas en un acto político que es verdad que se dijeron muchas más cosas de lo que se resaltó

primero dice que el gobierno vasco no está para crear empleo

que ustedes lo que hacen es crear oferta pública que poca todo hay que decirlo y luego

internacionalizas tu formación entonces cuando pasa todo eso que es verdad señor damborenea que esto no es de la generación de los que han nacido en los ochenta o en los noventa

hay que reconocer que ahora hay mucho más desde que empezó la crisis económica

y como decía la señora zulaika en el dos mil uno había

es un problema pero no un problema únicamente para esos jóvenes que se marchan

o no encuentran una situación económica parecida que le resuelva sus planteamientos de vida o simplemente porque empiezan un proyecto vital en otro lugar

y que hay que formarles y que hay que darles oportunidades y que tienen que estar cargados de esa formación esas formaciones mejor formadas y licenciados

pues resulta que el gobierno vasco no termina de proponer nada y a dónde quiero llegar con todo esto quiero llegar con todo esto quiero llegar con todo esto a que me parece que la ley de juventud

ley de juventud cuando todas las comunidades autónomas o casi todas aragón andalucía canarias baleares castilla y león navarra valencia cataluña la rioja ya tienen ley de juventud

desarrolló una ley de juventud porque era demandada por los colectivos jóvenes su consejo de la juventud y el gobierno entendió que debía tenerlo pues el pnv se empeña en que todo lo que pase por encuadrar algo dentro de la ley de juventud es no y es verdad que nosotros en la legislatura en que patxi lópez fue lehendakari trajo un proyecto de ley por un problema más político que relacionado con la juventud acabó no saliendo pues nosotros siempre hemos creído que la ley es una herramienta necesaria no vamos a engañar a nadie ni hacernos trampas en el solitario una ley de juventud vasca no es la panacea y no va a solventar todos y cada uno de los problemas que tiene la juventud o sea somos consientes que la ley de vivienda no soluciona todos los problemas de vivienda de la comunidad autónoma pero entendemos que es una herramienta fundamental por qué porque da cobertura legal y por tanto

podrían estar enmarcados dentro de ese instrumento legal porque se exigiría a los gobiernos que hicieran políticas concretas

exige el compromiso obliga al cumplimiento y ordena la política para dar soluciones como digo efectivamente todo no se soluciona en una ley de juventud pero es verdad que hoy por hoy

que intenta desarrollar junto con los ayuntamientos y las diputaciones a través de planes que se desarrollan dentro de la administración que los ayuntamientos reconozco que hacen lo que pueden dentro

pero acaba difuminándose un poco qué es lo que hay que hacer verdaderamente con este colectivo que hoy pues debiera ocuparnos más en mi opinión de lo que lo hace

casi cuatro años en los que hemos divagado hemos seguido hablando de este colectivo hemos seguido diciéndole no a una ley de juventud seguido escuchando al consejo de la juventud hacer informes sobre temas concretos también ha hecho sobre el tema del empleo y esos jóvenes que se ven obligados a marcharse y sin embargo una vez que se presenta ese informe que a mí me parece un informe duro en el diagnóstico

planteamos esto no hubo nada quedó se presentó en el parlamento

tenemos el observatorio de la juventud que hace informes sobre cada una de las situaciones que vive este colectivo la dirección de juventud nos explica todos y cada uno de los programas

qué es lo que se hace qué es lo que este gobierno ha hecho para que los jóvenes

si tienen oportunidad y deseos de hacerlo que lo hagan pero no se ha hecho nada

y usted el otro día a la moción de la señora

en planes de empleo pero si el gobierno vasco tuviera que poner en una línea un guión otro uno detrás de otro

pues creo que ustedes tendrían más de un problema porque si no o ustedes no saben explicar

porque a esa ponencia ha venido gente de la universidad han venido por supuesto colectivos de jóvenes emprendedores

ha venido gente del ámbito del euskera en la universidad han venido organizaciones feministas

menos las organizaciones políticas que ya sabemos lo que opinan porque cada una habla más con las nuestras pues ya sabemos lo que opinan

que se le invitó una vez y estábamos dispuestos a que viniera otra vez y al final nadie

es capaz de reconocer algo que se haya hecho para que esto mejore y entonces

decir lo de salgan fuera que está muy bien aunque el señor toña les había dicho lo contrario y luego les dicen

el trabajo de las empresas y el gobierno lógicamente tiene que ir de la mano es

países huyendo del mileurismo y ahora algunos se van porque ni siquiera lo del

por tanto ante cinco mil jóvenes que se han ido en la crisis económica ante la mitad de la población joven que tenemos

es capaz de hacer informes para decir que efectivamente todo está de pena cada una de las organizaciones cada una de las universidades dicen hay algo que falta en nuestra opinión la ley probablemente no sea la panacea pero lo que yo creo es que el país vasco no puede pasar más años sin esa herramienta legislativa

los cumplimientos respecto a este colectivo por tanto la enmienda firmada con el grupo eh bildu por un lado

y el segundo punto habla de la necesidad de esa herramienta legislativa efectivamente y con la realidad política que tenemos hoy en esta cámara

la transacción porque el tema de la ley pues es algo que ustedes ya nos explicará en algún momento por qué

por hacer esta ley que en el fondo ustedes como nosotros sabemos que les obliga demasiado y por eso probablemente no les guste

compartimos con usted que la creación de oportunidades de empleo para las personas jóvenes debe ser una prioridad

esandakoak errepikatzeaz gain eh bilduren ekimenean ez da inolako proposamen zehatzik egiten la prioridad es posibilitar la creación de empleo de calidad y para eso es fundamental mantener y adoptar medidas para incrementar el crecimiento económico

por mucho que le pese este plan ha comenzado a dar sus frutos mes tras mes estamos creciendo se están creando oportunidades de empleo bi mila hamaseiko aurrekontuetan

del mes de abril han sido buenos pero en ningún caso nos conformamos

para el partido nacionalista vasco vamos a favorecer la creación de ese empleo y es una prioridad baina bide luzea dugu aurretik hainbat ekimen

pero contesteme solo a una pregunta usted entiende por política económica industrial atractiva la que llevan a cabo las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular

egiteko el partido nacionalista vasco lo tiene claro nuestra política económica se orienta a construir una sociedad competitiva y justa zulaika andrea

de su ley para no perder esta tarde baina pseren zuzenketa eta erdibidekoa ikusteak atzera begiratzeko parada ere eman digu he vuelto a recordar

un proyecto de ley que no garantizaba el objetivo que pretendía un proyecto de ley que no recogía medidas para garantizar la autonomía de las personas jóvenes y muchísimo menos la emancipación

un proyecto que vulneraba las competencias de las instituciones vascas lleno de objeciones y reparos en su expediente administrativo al que se presentaron diversas enmiendas a la totalidad

por tanto señora rojo no se equivoque aquello no fue un problema político aquello lo que

jurídico la enmienda a la totalidad presentada por nuestro grupo es la única

la única que tiene su vista puesta en el trabajo a desarrollar desde las distintas administraciones de cara a facilitar la emancipación de las personas jóvenes en el primer punto del la enmienda instamos al gobierno vasco a seguir trabajando junto con el resto de instituciones nuestro grupo sí cree en la colaboración interinstitucional a diferencia de lo que hemos escuchado en otros grupos

y a seguir colaborando con las empresas vascas y las instituciones educativas para facilitar la inserción laboral de las personas jóvenes además en el segundo punto

integrales queremos políticas de juventud que partan de una convicción bien clara

así como del de euskadi de su desarrollo social y económico asimismo a las instituciones a que desarrollen políticas y estrategias que favorezcan la emancipación de las personas jóvenes incidiendo sobre todo en dos ámbitos el empleo y la vivienda empleo y la vivienda

a la hora de poder emanciparse y desarrollar un proyecto de vida independiente horregatik guztiagatik ez dugu inolaz ere erdibideko zuzenketa babestuko

podemos efectivamente recordar algunos de los datos que aparecen en la justificación de la iniciativa o en el texto de la interpelación presentada en su momento por eh bildu para efectivamente

en euskadi basta con recordar que la tasa de empleo supera con creces el treinta por ciento que el sesenta por ciento de la juventud no tiene ingresos que en álava bizkaia y gipuzkoa seis de cada diez personas que viven en la pobreza son menores

que el veintidós por ciento de las personas jóvenes con trabajo no llega a fin de mes que el noventa y cinco por ciento de los contratos que se les hace a las personas jóvenes son temporales y el cuarenta y dos por ciento son de menos de un año o que la brecha salarial es de unos ocho mil euros anuales entre las personas jóvenes y el resto

trabajadoras creo que con estos datos podemos llegar a la conclusión de que el gobierno vasco actual ha fracasado en lo que se refiere a la lucha contra el desempleo

hay mucho trabajo que realizar y por lo tanto es conveniente reconocerlo y en ese sentido también es conveniente que la portavoz del grupo nacionalistas vascos no lance las campanas al vuelo no haga esa propaganda gratuita del gobierno o incluso quizás

grupos de la oposición gracias a los cuales supuestamente la enmienda transaccional

cada uno hace el discurso que considera yo voy a intentar

acordado que era lo que se proponía en un principio y que era lo que finalmente se nos ha propuesto a través de una transaccional

que reprobáramos las declaraciones realizadas por el lehendakari y yo no puedo reprobarlas las declaraciones realizadas por el lehendakari porque estoy básicamente de acuerdo con lo que él dijo

una política juvenil que pueda ser considerada como una política integral y se nos apunta a la conveniencia de reconducir la política juvenil pero en fin sin ninguna medida concreta

debemos reprobar las declaraciones realizadas por el lehendakari aunque finalmente no sabemos si los grupos proponentes están de acuerdo con lo que dijo

realmente sí lo que no comparten es la política efectivamente llevada a cabo pero

que aprobemos una ley de juventud me parece digamos una transaccional con muy poco contenido como para que pueda ser apoyada al menos por parte de upyd qué es lo que

pues dijo que pensar en salir al exterior

a euskadi y como diría un antiguo lehendakari qué hay de malo en ello quién no puede estar de acuerdo con estas declaraciones no

haya un dirigente político en que realice efectivamente estas declaraciones porque en muchísimas ocasiones salir al extranjero

no solamente vital y laboral y creo que el lehendakari se refería a eso por lo tanto entiendo que el lehendakari no pretendía expulsar a los jóvenes vascos

puede ser una buena oportunidad para aprender adquirir conocimientos ganar en experiencia y luego volver si efectivamente existen aquí

y los jóvenes que marcharon optan por ese camino y además porque muchos ni siquiera quieren volver yo creo que por lo tanto el lehendakari se refería a esto con lo cual

vayamos a apoyar la reprobación de unas declaraciones que en el fondo todos ustedes han comprendido y creo que

compartimos todos tenemos amigos familiares o conocidos que han optado por salir fuera el drama no es salir al extranjero sino que aquí no exista empleo

se puede hablar de las políticas de empleo se puede hablar de qué medidas articulamos para luchar contra el desempleo de eso se puede

ya digo que nosotros no vamos a reprobar las palabras del lehendakari porque además en el año dos mil doce el anterior lehendakari lópez dijo parecido repasando noticias semejantes leo aquí en un medio de comunicación cómo el lehendakari el veintiocho de marzo del dos mil doce

a los miembros del consejo asesor para asuntos socioeconómicos el desarrollo de una posible iniciativa para promover oportunidades de cualificación de jóvenes profesionales en el extranjero y entiendo que el lehendakari lópez no pretendía que los jóvenes

con lo cual en fin ya digo que no comparto lo que se plantea por otro lado el consejero durante el debate de la interpelación señalaba que

tener oportunidades aquí lo ilusionante es que tengan la opción la oportunidad de tener una experiencia internacional una experiencia en las empresas vascas en el exterior o en empresas que le aporten valor experiencia

que les permita desenvolverse en el ámbito internacional y nosotros compartimos también estas declaraciones del señor consejero por lo tanto creo que la transaccional

para perjudicar al gobierno o para reprobarle determinadas declaraciones creo que no aporta nada

reprobar al lehendakari por sus afirmaciones porque estas afirmaciones las compartimos

con una ley de juventud son medidas de mucho calado que habría que impulsar medidas de reactivación económica planes para incentivar la creación de empleo joven seguramente también una ley de juventud pero desde luego como medida accesoria invertir más en lo que tiene que ver con inversiones productivas

o también medidas que puedan decidirse en la ponencia de juventud que lleva en marcha varios años en este parlamento esto sí sobre esto sí se puede debatir sobre esto sí

reprobar las declaraciones del lehendakari para nada no lo compartimos compartimos de hecho las declaraciones del lehendakari gracias eskerrik asko maneiro jauna

respecto al señor damborenea bueno nosotros decíamos y de hecho hemos incluido en la enmienda transaccional

usted en que no solamente tengan que volver las personas jóvenes con talento sino que queremos que vuelvan todas las personas que se han marchado y que evidentemente quieran volver algunas

seguramente no quieran volver y para eh bildu es importante porque sabemos nosotros

y casi casi como libro de noche revisamos constantemente los programas de empleo

ante los datos y ante la situación que no la décimos nosotros que el diagnostico está ahí

señor damborenea en que creemos que vuelvan todos las personas los mecánicos que se han ido también

mucho mejor hay algunas personas que se han ido que encima están fuera

queremos que se pongan recursos también para estas personas una ley un marco jurídico

que se cumplan los derechos de las personas jóvenes

incluyan dentro de ese marco legal respecto

nosotros no estamos en contra de la internacionalización siempre y cuando evidentemente los centros de decisión y tal

internacionalización de las empresas eso lo quiero dejar claro porque es verdad que en la respuesta del señor lehendakari en la interpelación que le hicimos también decía eso no estamos en contra no estamos en contra de las global training por ejemplo

que compartirá conmigo y con el resto de que la situación es grave

llegamos ante la situación en la que estamos pues eso

pues bueno pues para algunos seguramente que es una oportunidad pero es que nos parece grave es que creemos que

que lo que se ha hecho hasta ahora ya sabemos lo que se ha hecho pero que es insuficiente es que

es insuficiente lo que se ha hecho que es necesario hacer más y eso nos parece grave que se suelte

que evidentemente para algunos que se marchan es una oportunidad y vuelven con muy buenas experiencias yo no lo voy a negar pues claro que sí pero hay que hacer mucho más y eso pues para los que quieran y los que quieran acceder a las

las políticas de juventud de un gobierno ante la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir

el drama no termina aquí no es que haya diez mil personas jóvenes que se han marchado fuera es que esto se va a agravar

y gracias a que están las familias que están sosteniendo esas personas

y por ejemplo hay muchas más cosas más allá de los planes de empleo que se pueden hacer que se podrían hacer por ejemplo que esas personas tengan derecho a la rgi que no están teniendo y cuando la familia falla o si la familia falla qué pasa de esas personas el otro día por

organizada unas jornadas técnicas organizadas por la fundación eragintza sobre enfermedad mental e inclusión laboral la señora la directora de activación laboral

decía entre los programas que explicaba dirigidos a las personas con diversidad funcional

porque las personas que no tienen recursos necesitan tener recursos y cierta autonomía en la búsqueda activa de empleo por qué para los jóvenes no no sé yo creo que hay muchas cosas que todavía se pueden abordar nosotros decíamos bueno dicen que pasamos de intentar pedir algo en concreto

dos meses mi compañera belen arrondo creo que también presentó una iniciativa

un fondo de quinientos millónes de euros sobre todo y especialmente para los jóvenes y para las mujeres para

otras veces porque nos quedamos cortos no sabemos cómo acertar pero entendemos que algo hay que hacer que es urgente hacer algo y lo que hay pues igual una ley es la forma de garantizar estos derechos eh bildu nunca ha estado en contra de hacer una ley de juventud es más en su programa electoral

porque nosotros y yo también desde fuera aunque no estaba aquí desde fuera me ví muy bien revisé muy bien la ley de juventud y no solamente aralar eusko alkartasuna también creo que presentó

de aquella ley de juventud estamos en contra de la ley que trajo el pse entonces no en contra de que se haga una ley de juventud ni mucho menos y por eso también hicimos

que el resultado de esa ponencia tendría que ser en su caso hacer una ley de juventud y recoger las bases necesarias para que el gobierno tomara de referencia hacer esa ley de juventud junto con el resto

el voto de esta enmienda porque bueno creemos que es urgente hacer algo

claro que es urgente hacer algo lo que pasa es que la señora berriozabal está muy cómoda en el debate este de la nada que estamos teniendo este de las políticas de la juventud y tal

decía que estaba en contra de nuestra enmienda que dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a restablecer porque es que antes se hacía

y su gran argumento es decirme si son las mismas políticas que hace el partido popular en otras comunidades autónomas no gracias

mujeres de veinticinco años hoy trabajando en madrid que aquí yo yo hoy sí

a esas charlas que daba el señor pedro luis uriarte de cómo la comunidad de madrid ha ido creciendo ha ido creciendo ha ido creciendo ha ido creciendo

no sé si usted se ha enterado de algo a lo mejor teníamos que copiar algo no lo sé

si ya sé que estamos en la política del hacer que se hace y seguir sin hacerse nada

a cumplir sus presupuestos y planes de empleo juvenil

ala qué atrevimiento venimos a pedirle al pnv que cumpla

cómo nos van a votar a favor por favor esa es nuestra enmienda esa es nuestra enmienda por eso le he dicho que nosotros no íbamos a ser

de la juventud una persona de veinticuatro años veinticinco años no es un joven

no es una persona mayor adulta a la que evidentemente esta comunidad autónoma que ponerle los medios para poder tener empleo aquí y nosotros ya sabemos que eso no se hace con una ley

crear poco entorpecer mucho y aquí estamos asistiendo al debate del hacer que se hace y este gobierno ha sido un experto a lo largo de esta legislatura en hacer que se hace no sé cuántos planes de industrialización de reindustrialización de fomento de la no sé cuántos

con los mayores ingresos fiscales que íbamos a tener con la reforma fiscal porque bueno el fraude fiscal se iba a acabar íbamos a recaudar miles de millónes de euros en esta legislatura

también se presta al juego este de hacer que se hace es decir vamos a hacer que hacemos mucho por el empleo

y reprobamos las palabras del lehendakari que las palabras no son reprobables como ha dicho el señor maneiro están erróneas en el

para eso hay que darles los medios para que puedan volver no basta con querer oiga todos queremos que vuelvan pero habrá que poner los medios y eso es lo que nosotros no vemos en este gobierno

estamos en el debate de hacer que se hace y es evidente que una ley no va a ser la panacea de todos los males de los jóvenes

ni de la mitad ni de ninguno y menos cuando estamos hablando

y a ver si dejamos de tratar a los jóvenes como no sé qué cosas pequeñas porque una persona ya de veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco años habría que tratarle

tengo claro lo que mi grupo ha firmado en contra de las declaraciones del señor urkullu y totalmente de acuerdo en que euskadi necesita una ley estoy

y ahora le diré señora berriozabal efectivamente la pasada legislatura el gobierno de patxi lópez trajo una ley pero no era el primer gobierno que traía una ley

que nacía con el gobierno de ibarretxe a punto de terminar y que ustedes saben perfectamente cómo se hizo esa ley y cuál fue el desarrollo de esa ley y como ustedes solo apoyan leyes que nacen de ustedes pues obviamente a la de patxi lópez no a la del señor ibarretxe sí yo me he leído los debates que llevó la señora corrales y usted misma la pasada legislatura

es que la ley que de la pasada legislatura no resolvía el problema de la emancipación lo que no lo hacía era el proyecto que ustedes plantearon hace dos legislaturas solo hablaban de ocio y tiempo libre eso es lo único que planteaba el pnv para los jóvenes vascos y reconocido no solo por el pse sino por colectivos que trabajan con los jóvenes

otra cosa y que era la primera vez que se hablaba de desarrollo formativo desarrollo laboral experiencia y posibilidades de emancipación real pero como no vamos a volvernos nosotras en esta edad que tenemos abuelas cebolletas pues casi de hoy para adelante para eso estamos aquí

o que lo que nos hubiera gustado ser y no ha sido bien pues entonces el grupo socialista en esta legislatura ya fuera del gobierno que es lo que ustedes querían y por lo que les salía urticaria

para nosotros la ley de juventud una prioridad para vosotros totalmente salvable y traemos al parlamento un debate para traer la ley de juventud sea una realidad entendiendo

que el motivo para el no del pnv era el contenido de la ley que me lo quiero creer les pedíamos que lo hicieran no les decíamos qué tenía que contener el proyecto

decíamos el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que elabore una ley de juventud punto y también dijeron que no y usted cuenta la historia un poco como quiere porque efectivamente la ley de patxi lópez tuvo unos recursos

como siempre y casualmente la comisión arbitral les dijo que no tenían razón y salvó los recursos puestos a la comisión arbitral por invasión de competencias a otras comunidades autónomas

y usted sabe igual que yo que ese proyecto de ley se trabajó con las diputaciones con los ayuntamientos y con las

pero ustedes como eran protagonistas de la situación dijeron que no

que era una reformulación de lo que hay porque hombre si alguien es amigo de crear chiringuitos precisamente el pnv aquí en fin nos puede contar muy bien cómo se hace el tema y luego decir que efectivamente el drama de los jóvenes no es salir a formarse claro que no

porque donde te quieres quedar no tienes oportunidades por tanto no hagamos demagogia no estamos diciendo que está mal que alguien se vaya a madrid

y si quiere quedarse que se quede pero seamos capaces desde las administraciones de ofrecerle a ese colectivo señor damborenea que usted sabe que

pero usted sabe que la necesidad de uno de dieciocho de veinticinco no es la necesidad de usted

pero las necesidades de los proyectos de vida y de lo que cada uno se plantea no es igual

somos unos privilegiados quienes tenemos un trabajo y son personas que viven una situación de obligada salida al exterior los que son incapaces

de esos estamos hablando entonces no pongamos como que los que firmamos esta enmienda

plantear soluciones y propuestas para que quien quiera quedarse tenga una oportunidad

abran las puertas de las empresas del país vasco a los jóvenes que no y entonces como todos estamos rodeados de jóvenes y como les vamos a hacer trampas en el solitario porque todos conocemos la realidad

lo único que pedimos es que creemos que la ley es la herramienta fundamental

y a partir del texto que ustedes nos presenten trabajemos todas las fuerzas políticas en común a través de enmiendas parlamentarias para poder llegar a un acuerdo para que se solvente esta demanda

el psoe o quien gobierne lo que esta claro es que los que presumimos de ser los pioneros en todo somos una comunidad autónoma que no tiene ley de juventud y entonces a la juventud habrá que darle una respuesta

con decir una cosa lugares comunes igual que lehendakari lugares comunes titulares de periódico planes y planes

nada transversalidad nada políticas concretas nada

eso es lo que le estamos ofreciendo a la juventud vasca estoy absolutamente de acuerdo con quien quiera salir salga pero también estoy de acuerdo con quien quiera quedarse que el gobierno sea capaz de plantear las posibilidades de hacerlo

que yo tenga que decir que el empleo lo crean las empresas que el gobierno no crea empleo más allá de las ofertas públicas de empleo pues hombre pues eso creo

que el gobierno vasco no crea empleo el gobierno vasco crea el empleo a través de ofertas públicas de empleo mucho o poco lo que le permite el partido popular pero más allá el gobierno no crea empleo el empleo lo crean las personas

la economía y posibilitar la generación de oportunidades de trabajo y señor maneiro creo que no he sido yo quien ha lanzado las

los datos de los últimos meses son bueno han mejorado pero que al menos hay que favorecer la creación de

señora rojo el partido socialista tiene una terrible obsesión

tuvieron una muy mala digestión de la decisión de este parlamento de devolver el proyecto de ley al gobierno pero nosotros entendemos que las leyes son instrumentos no son fines en sí mismo

usted ha hablado de muchas cuestiones de entonces no quería ser abuela cebolletas pero creo que

ustedes pretendieron hace un instituto de la juventud de euskadi

no solo estaban dispuestos sino que recogieron un proyecto de ley que se iban a saltar a la torera todas las normas que ustedes mismos se habían dado respecto a la creación

ustedes crearon la norma y ustedes mismos se la saltaban en un proyecto de ley

ha sido adquirir junto con el partido nacionalista vasco un compromiso por la reactivación económica y la generación de empleo voluntad y compromiso

desde luego aquello que presentaron como la panacea de la emancipación no servía para nada eta zulaika andrea berriz diotsut

y el señor damborenea bueno ya le he dicho que desde luego nosotros no compartimos lo que hacen las comunidades gobernadas por el partido popular

la inasumible política energética que dificulta la competitividad de nuestras empresas un país que cree en la industria no puede aceptar la política tarifaria actual

la política económica del partido popular es por ejemplo un gobierno español que no tiene un ministro de industria en ejercicio que no defiende su posición en europa que no trabaja por la economía productiva

esa es la política económica del partido popular esa es la política económica de la que usted presume y desde luego usted dice que

y el suyo es el de vamos a dar a entender que no se hace

en primer lugar porque no compartimos su modelo de política económica industrial y en segundo lugar

los presupuestos el gobierno los gestiona y ya los cumple por tanto es imposible que nosotros votemos a favor

gracias señora presidenta buenas tardes señorías presento esta proposición no de ley en nombre del grupo popular referente

sí señorías estamos en el año internacional de las legumbres porque así lo declaró la onu en el año dos mil trece con un objetivo claro

y favorecer su producción como alimentos sostenibles

forman parte de una dieta saludable para reducir la obesidad y contribuyen a controlar enfermedades como la diabetes o afecciones coronarias es un cultivo sostenible las legumbres

contra el cambio climático sostenibles en la producción utilizan poco agua para su producción fijan el nitrógeno por lo que contribuyen

de abonos nitrogenados lo cual provoca una disminución de emisiones de gases a la atmosfera son sostenibles

se almacenan durante largos periodos sin necesidad de refrigeración u otros tratamientos no necesitan transformación alguna el trabajo de procesamiento es mínimo ya que se reduce

tienen una huella reducida de sobrantes alimentarios

hablamos de un problema de desperdicio y residuos como no hace mucho tratamos en esta cámara y a pesar de todas las bondades que aportan

el volumen de producción por eso entre los retos de este año internacional de las legumbres dos mil dieciséis está aumentar el consumo de legumbres

de legumbres es de tres kilos por persona al año en el año dos mil era de cuatro kilos por persona son las nuevas generaciones quienes no han incorporado a su dieta las legumbres este alimento está discriminado dentro de la dieta mediterránea igual que los cereales

según los nutricionistas lo ideal es tomar dos raciones a la semana dato que no se cumple en ninguna comunidad autónoma y tampoco en el país vasco

internacional de las legumbres dos mil dieciséis es mejorar el volumen de producción la cantidad y también la calidad en cuanto a la cantidad para dar un dato de evolución de producción en álava por ejemplo hace aproximadamente cien años álava tenía una población de treinta y dos mil habitantes la producción de alubias en ese tiempo fue

hablando del año dos mil quince la población de álava está en torno a trescientos veinticinco mil habitantes la producción de alubia del año dos mil quince fue

hagan números y verán el volumen de consumo y de producción cómo se ha reducido somos

menos legumbres en cuanto a la calidad hay que decir que estamos en un alto nivel y contamos con expertos productores

calidad kalitatea desde el año noventa y nueve para la alubia de tolosa

además tenemos la marca de calidad de euskal baserri

de origen producidos en pequeñas explotaciones familiares próximas a los núcleos rurales

es mucho lo que se puede hacer lo que podemos hacer en nuestro ámbito en el país vasco son muchas las acciones que se están promoviendo

desde el grupo popular hemos estado en contacto con productores con cooperativas y ellos tienen varias iniciativas en mente

este trabajo y acercarlo a los ciudadanos especialmente a las nuevas generaciones

métodos de producción variedades la calidad de nuestros productos además es un producto alternativo o que puede rotar con otro tipo de cultivos con lo cual genera una dinámica interesante en el sector agrícola señorías

del grupo socialistas vascos que hemos llegado a una enmienda de transacción que la tienen todos ustedes espero que los grupos que no han enmendado pues participen también de esta iniciativa que la voten a favor y lo más interesante es que este

declarado así hagamos una labor intensiva desde las administraciones con los productores con las cooperativas para divulgar su consumo los beneficios que aporta
y además lo que aporta al medio ambiente y a la actividad económica agrícola muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos el grupo socialista se suma a la declaración de la onu

bajo el lema semillas nutritivas para un futuro sostenible

crear conciencia de sus muchos beneficios y promover un producto y comercio

nuevo en la cadena alimentaria el papel de las legumbres cuenta con una gran aportación por su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional a cuidar la salud siendo un icono de la lucha contra la desnutrición si hablamos del cuidado del medio ambiente

no lo valoramos lo suficiente ayudan a mantener el medio ambiente con sus características que se incluye una baja huella de carbono ayudan en mejorar la fertilidad de los suelos actúan como fijadores de nitrógeno en la protección del suelo

y un cultivo intercalado fomentan la agricultura sostenible incrementan la biodiversidad las legumbres

la amplia diversidad genética permite seleccionar variedades adaptadas a los cambios que estamos notando cuentan con una menor huella de carbono

de efecto invernadero debemos hacer una apuesta importante por los productos locales fomentar la agricultura sostenible ofrecer
un suministro de alimentos de larga conservación isiltasuna mesedez deben servir de gran apoyo

y las ferias que todo sirva para ayudar y reconocer los productos locales como es la alubia pinta alavesa la alubia de tolosa la alubia de gernika bajo el label kalitatea

euskal baserri el interés de los agricultores por el cultivo de legumbres

y debe ser en aumento la incorporación de esta actividad en las explotaciones implica invertir una nueva maquinaria y de esta manera se debe comenzar con la ampliación de mayor actividad comercial algo que creemos muy positivo

en toda su diversidad fomentar el crecimiento la creación de empleo la base de un mejor acceso al consumo de los productores

la producción y la distribución de las legumbres aportan una serie de ventajas económicas ya que representan una parte importante y necesaria dentro del sector primario recomendando su incorporación en una dieta sana y saludable de forma especial

sería positivo seguir trabajando junto con la hostelería para promocionar y dar a conocer nuestros productos dar un valor a nuestras legumbres por medio de la rica y variada receta y gastronomía que contamos

y reconocimiento también sería de gran ayuda que el gobierno

desarrollando estrategias sostenibles que se basen en la implementación de un modelo agroalimentario que garantice precios justos tanto a los productores como a los consumidores asegurando la trazabilidad

de las legumbres producidas en nuestra comunidad ayuda

incrementado su producción y que sirva de ayuda

a los retos existentes en el comercio votaremos a favor de la enmienda transada con el partido popular

que recoge las aportaciones que el grupo socialista ha realizado en apoyo y reconocimiento al año internacional de las legumbres dos mil dieciséis
nada más y muchas gracias eskerrik asko fresno anderea

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi siempre toca la agricultura el último punto del orden del día

pero hoy ni es su cumpleaños ni tengo ganas de que estos señores salgan antes con lo cual hoy me voy a explayar porque el tema merece la pena

que más vale una comida de legumbres con amor que ternera con odio y hoy aquí hay amor mucho amor señora lópez de ocariz como debió haber amor en la asamblea general de la onu del veinte de diciembre del dos mil trece aquellos diplomáticos decidieron declarar el año internacional

y lo hicieron con la siguiente argumentación la leo porque esta no me la he aprendido de memoria observando que las legumbres son cultivos leguminosos anuales

que se utilizan para alimento y forraje y que el término legumbre se limita a los cultivos cosechados exclusivamente para grano seco

bien se pusieron de acuerdo en algo que no estarán de acuerdo los botánicos porque llamar al guisante verde verdura me parece un poco fuerte pero bueno excluyeron y tiene algo que ver con lo que viene después porque luego argumentan

correcto siguiente y además todas las organizaciones mundiales de la salud nacionales y regionales la recomiendan porque evita la obesidad

perfecto y luego añaden otra cosa que es la fundamental de este año dicen celebrar un año de las legumbres servirá de oportunidad

utilizar mejor las proteínas derivadas de las legumbres fomentar su producción mundial

lo resuelven con un presupuesto que dicen que no hay pero que aceptan aportaciones voluntarias incluso del sector privado mucho año mucha legumbre y poca pasta pero

dicho y hecho ya estamos en el año internacional de las legumbres y cómo lo celebramos podía ser con un juerga se me ocurre lo primero pero en un sitio tan circunspecto y serio como este parece que no

tampoco usted viene con una pnl para celebrarlo

lo que dice al gobierno haga usted una serie de deberes pero además

en un mes aquí corriendo claro piense que la declaración de la onu es mundial

nosotros somos muy importantes incluso bilbao tiene un mapamundi pero vamos a ver el contexto real de legumbres en el que nos movemos usted más o menos lo ha dicho yo vi la estadística del dos mil catorce producción de legumbres ciento cincuenta y cuatro mil kilos de alubia label cuarenta y dos mil de alubia euskal baserri

de garbanzo pedrosillano catorce mil quinientos de habas doce mil de lenteja

doscientos treinta y cinco toneladas gutxi gorabehera dos camiones de tres ejes toda la producción de legumbres de euskadi

primera misión podemos producir más podemos

de dos mil diez a dos mil catorce hemos duplicado la producción es decir sin año internacional sin pnl sin consejera que venga tenemos el doble de producción y de superficie

la realidad se han puesto a trabajar y lo están haciendo y eso está muy bien ahora cuánto tenemos que ponernos a producir si nos vamos al área soberanía alimentaria como producimos creo que ciento dieciocho gramos por ciudadano a año y consumimos un poco más de tres kilos

tendríamos que llegar a seis mil seiscientos toneladas año que son seis mil cuatrocientos hectáreas que ya son

vamos promocionando pero tenemos que desplazar otros productos como la remolacha que ya está ocurriendo un poco en álava cómo lo arreglamos el año internacional de la remolacha

y así nos vamos poniendo de acuerdo en sus siguientes años internacionales bien mientras

con la declaración del año internacional y

menos las habas que como son de pienso animal todavía los terneros no han pedido

todo ocurrirá entonces a partir de ahí incrementaremos el consumo y compraremos de otros sitios

realmente el objetivo del año internacional de las legumbres declarado por la onu es un gran programa mundial de cooperación al desarrollo donde

se prevé que se incremente algo el consumo en los países ricos y hagamos una transferencia ellos de productos agrarios y nosotros a ellos de dinero me parece un gran programa

ni es una venida de la consejera de desarrollo económico del gobierno vasco aquí es un programa de cooperación al desarrollo eso hubiese merecido una declaración institucional si le parece poco le adjuntamos unas recetas de legumbres que hay muchas

yo estoy dispuesto si me deja votar por puntos a votar el primero

su propuesta inicial era la correcta que este parlamento se adhiere al año internacional no que le pedimos al gobierno que se adhiera si hay que pedirle que se adhiera y qué hace el parlamento este con el año internacional

y yo apuesto por esa adhesión no obstante yo votaré el primer punto si me deja y no obstante diré que el grupo nacionalistas vascos se adhiere

a partir de ahí la propia declaración de la onu las propias declaraciones institucionales los reportajes que están saliendo todo eso está ya moviendo al consumo de legumbres es una gran publicidad mundial es lo que se pretende realmente

es otra cosa y aquí seguramente en euskadi se incrementará algo el consumo de legumbres a partir de ahí también nosotros tenemos una costumbre inveterada

las legumbres con productos del cerdo ya el aspecto de salud

a parte que tiene otros efectos indeseados que participan

mientras tanto en euskadi sigue incrementándose las oportunidades el crecimiento el sector va estando el gobierno está financiando proyectos de investigación desarrollo

no hace falta que nadie venga a explicarnos planes todos sabemos que se está promocionando label y euskal baserri en ferias en anuncios etcétera etcétera

dejemos que el año internacional de las legumbres haga el trabajo que tiene que hacer con el objetivo que pretende hacer y no nos liemos más y no aprovechemos el viaje para otras cosas porque puestos a celebrar por qué no celebramos el trece de marzo que es el día mundial del beso

decidió que todos los años sea el día mundial de la felicidad

y la cosa transcurre normalmente por cierto el año dos mil trece

fue el año internacional de la quinoa y aquí ni nos enteramos

desde el dos mil trece hasta el dos mil quince prácticamente

y no intentemos hacer anuncios y publicidad aprovechando otros viajes mire ya lo dijo

no hay seguridad de que sea bien visto en cualquier caso
que vivan las legumbres muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

la enmienda que ha presentado y al acuerdo al que hemos llegado que nos parece muy importante

a que se vote por puntos y señor tellería usted mismo el año dos mil ocho fue el año internacional de la patata

prácticamente por lo tanto usted se queda con su perra gorda y nosotros seguiremos con nuestras iniciativas creo que no hace ningún daño el que

al revés hemos hablado con los productores con las cooperativas

aprobación de que traigamos una iniciativa y le he dicho cuáles son los aspectos que ellos creen necesarios pero yo le respeto mucho su criterio

no nos oponemos a que se vote por puntos y por lo tanto creo que es tan interesante o más que muchas iniciativas que hemos tratado

hosco en la intervención nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

eskerrik asko señora lópez de ocariz a ver si la patata ha desaparecido porque aquí no aprobamos

de los años internacionales de los distintos productos de hortalizas y verduras que haya en el mundo

estamos hablando de un sector todavía pequeño que se ha duplicado en cuatro años sin que nadie apruebe nada

no era mi intención ser hosco en esto otra cosa es que no le guste lo que yo haya podido decir pero creo que el contexto de un año internacional

es un contexto mucho más amplio y mucho más complejo
que el que esta cámara le llame a la consejera para que nos venga a decir qué publicidad va a hacer de los garbanzos los próximos años muchas gracias eskerrik asko tellería jauna